la política en el nivel municipal es la más próxima a la vida cotidiana de la ciudadanía es un espacio de acción política clave para impulsar y generar cambios tangibles

por eso las administraciones locales nuestros municipios nuestros ayuntamientos son una pieza angular para construir modelos de vida sostenibles e igualitarias modelos de vida donde la justicia social sea pilar angular y esa pasa

son las instituciones más cercanas desde las que pensar y gestionar los

lo que como comunidad necesitamos para disfrutar de vidas dignas de ser vividas y las que ofrecen toda la potencialidad para el ejercicio de la participación ciudadana

apoyar y acompañar las medidas y políticas que se promueven desde los municipios

dos días de conformarse los nuevos gobiernos municipales euskadi tendrá

en estos próximos cuatro años desde el gobierno vasco este tiempo de relevos y cambios se puede afrontar

transiciones institucionales pero tendría que tener en cuenta que

ha redoblado sus reivindicaciones y sus propuestas las mujeres han desbordado en dos huelgas históricas consecutivas de forma incuestionable las calles de todos los pueblos y ciudades de toda euskadi por lo tanto el punto de partida y las metas de los nuevos

no pueden de ninguna manera ser iguales que en dos mil quince deben escuchar y hacerse eco de lo que se viene reflexionando y proponiendo desde la academia las organizaciones y las políticas de mujeres y feministas la forma en que se han organizado los pueblos

la mayoría de ellas históricamente se han pensado desde la perspectiva de un sujeto universal que tradicionalmente se manifiesta en un hombre blanco joven sano

planificar desde un modelo único conlleva no visibilizar y no reconocer todas las formas de vida y las necesidades de la ciudadanía

y con ello explicitar y buscar acomodo a la cobertura y el ejercicio de los derechos de todas y de todos construir pueblos y ciudades desde una perspectiva feminista es también por la puesta en valor de otro modelo de desarrollo más sostenible

último que las personas vivamos mejor y de una forma más compartida diversa corresponsable y generadora de derechos así que ante una nueva etapa de administraciones locales en lugar de

se puede afrontar este relevo institucional como una ventana de oportunidad para que estos últimos cuatro años de consolidación de los feminismos y de nuevas propuestas políticas

el reflejo en los próximos cuatro años por ello hay que salir de esa zona de confort

hay que tener voluntad política compromiso firme con los derechos de la mitad de la ciudadanía

responsabilidad y ejercer el liderazgo que asigna la ley al gobierno vasco

y que aproveche el nuevo impulso municipal para promover más y mejores políticas en los próximos cuatro años por eso poniendo en marcha las competencias que se le asignan en la normativa de igualdad sin salirse de su rol ni invadir la autonomía municipal se pueden fortalecer las buenas prácticas y también se puede y se debe innovar para brindar a los ayuntamientos

nuevos impulsos debe dar cobertura de forma equitativa a todo el territorio de euskadi y debe intentar metas más ambiciosas

del gobierno vasco es imprescindible el artículo cinco de la ley de igualdad establece que el gobierno vasco tiene entre otras la competencia de planificación general y elaboración de normas y directrices generales en materia de igualdad de mujeres y hombres la ley de creación de emakunde define como fin

política económica cultural y social del país vasco y

del impulso asesoramiento planificación y evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la comunidad autónoma de euskadi

claras para los diferentes niveles institucionales como vemos hay herramientas legales para que se cumpla el encargo que le hacemos al gobierno vasco con esta iniciativa

de igualdad se vienen mencionando líneas de trabajo específicas para impulsar la igualdad desde el ámbito local

imprescindible acometer un nuevo impulso para las políticas de igualdad sin duda ponemos en valor el trabajo que se está haciendo desde los ayuntamientos y las redes pero si queremos avanzar no se pueden negar estos números nos parece que estos datos muestran claramente que hay debilidades en las políticas de igualdad en el nivel local

reforzar las buenas prácticas pero también impulsar nuevas medidas e innovar para apoyar y acompañar a las instituciones más próximas a la ciudadanía en el proceso de cumplir con los mandatos de la normativa y con el compromiso con la igualdad y la ciudadanía

y después de trabajo de mucho trabajo y mucho diálogo hemos logrado una vez más un acuerdo unánime para mejorar

la vida de las mujeres y en definitiva de toda la sociedad por eso en esta iniciativa que hoy vamos a aprobar instamos al gobierno vasco a apoyar las entidades locales de la comunidad autónoma de euskadi para que impulsen los instrumentos precisos para la consecución de una igualdad

como es que se establezcan en todos los ayuntamientos el cuerpo técnico de igualdad o estructuras de referencia así como programas de apoyo y acompañamiento a los municipios para la elaboración de los planes de igualdad y ordenanzas municipales en torno a la igualdad también aprobamos que

del papel de los ayuntamientos para reforzar los órganos para la igualdad

directa de la máxima autoridad de cada institución así como los recursos adecuados para llevarlos a cabo

como espacios para abordar las relaciones entre la institución y la ciudadanía y cómo no que esta se den con grupos feministas y de mujeres

interesadas instamos también al gobierno a elaborar junto con eudel diputaciones las directrices generales en torno a estas unidades de igualdad con el fin de que haya una uniformidad más o menos para que

ayuntamientos haya heterogeneidad en las estructuras en los modelos y en los recursos también instamos al gobierno vasco a dar cumplimiento de los diversos acuerdos aprobados en relación a las violencias machistas que se han dado en este parlamento y que todavía faltan por cumplir

prevención atención y protección así como a revisar y mejorar los protocolos con el objeto de proporcionar una atención rápida eficiente e integral

el tono el debate y el consenso al que hemos llegado todas las fuerzas políticas para aprobar hoy esta proposición no de ley eskerrik asko eskerrik asko

dituzten eskumenak edo garatu behar dituzten funtzioak hoy tratamos el tema de la igualdad en el ámbito municipal y como se ha dicho aquí

a los ciudadanos instituciones que obviamente desarrollan actuaciones que tienen que ver con la consecución de la igualdad real y efectiva son acciones de distinto tipo y como decía todas estas acciones vienen encuadradas o en el marco

la ley para la igualdad del año dos mil cinco en donde claramente se establecen las diferentes competencias y funciones que tienen cada una

institucionales en este sentido al gobierno vasco en colaboración con emakunde le corresponde la planificación general elaboración de normas y directrices

real y efectiva al mismo tiempo en el artículo siete se hace referencia a las competencias que tienen las administraciones locales

que recoge de forma coordinada y global las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos y en este sentido se contemplan diferentes medidas

bideratzen dira eta beharrezkoa den finantzazioarekin en este sentido como decía los ayuntamientos realizan actuaciones de forma individual de mancomunidades y contarán para ello

del gobierno vasco udaletxeek ekintza desberdinak bideratzerakoan

lo que se trata es de garantizar esa aplicación práctica y efectiva del derecho a la igualdad reconocida en los textos legales creemos que esta iniciativa

en el esfuerzo que hemos hecho de transar con las

se han incluido las peticiones del partido popular y por lo tanto creo que en ese sentido el acuerdo a nuestro entender

más completo en cuanto a algunos puntos específicos que planteábamos en nuestra

que se recojan las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres que el gobierno vasco remita la regulación comprometida

que también el gobierno vasco dé apoyo a las entidades locales de la comunidad autónoma vasca para que se impulsen aquellos instrumentos que son necesarios para la igualdad real y efectiva

y también otra cuestión que también la proponente ha hecho referencia y que reiteradamente hacemos referencia en este parlamento porque han sido muchos que el gobierno vasco cumpla y aprovecho que está aquí el señor

aprobados en esta cámara a lo largo de esta

efectivamente la ley de igualdad vasca fue pionera en su momento fue un texto legal que se convirtió en referente para muchas comunidades autónomas pero además

más ambiciosa y que toque aspectos que en aquel momento o no tocaban o no estaban tan presentes o al menos

otros logros que alcanzar la ley de igualdad la nuestra y la de otros lugares tiene un carácter general

tiene además un efecto expansivo sobre todo ese ordenamiento

a todos sus rincones la nuestra la de todos nace en una comunidad autónoma en un parlamento como este pero es verdad que los ayuntamientos también

cada una de las normas legales que aprobamos en esta cámara acaban afectando de una manera u otra a los ayuntamientos pero también es cierto que no todos son iguales

y ahí es donde debiera estar y donde debe estar el gobierno vasco

desde esta cámara para que así sea lo que hoy nos propone elkarrekin podemos lo compartimos en la filosofía y en la explicación que nos ha planteado la señora arana

que todavía existen carencias que todavía hay incumplimientos y que es cierto que se han dado muchos pasos pero que debiéramos de fijarnos en todo aquello que nos queda por alcanzar

la igualdad efectiva y real siempre desde el respeto competencial entendiendo por un lado el papel de los ayuntamientos y la ley municipal

y por otro lado las especificidades que tiene cada uno como he dicho antes de tamaño de presupuesto y de posibilidades reales de llevar a cabo esta obligatoriedad ahí está el papel de eudel y de las diputaciones que hemos sido capaces de reconocer en la enmienda

ni mirar para otro lado pensando que en el parlamento lo podemos hacer todo ponemos en valor el acuerdo desde el grupo socialista una unanimidad de partidos políticos muy diferentes

pero que desde la generosidad de las diferentes portavoces hemos sido capaces de consensuar coincidimos en la necesidad de seguir trabajando en la importancia de la ley

nos parece positivo trabajar en la modificación de este texto para hacerlo más ambicioso pero no dejar de mirar aquello que queda por cumplir con esta iniciativa se reconoce el trabajo en aras de la igualdad que realizan los ayuntamientos reconociendo sus diferentes posibilidades

porque se reconoce esta labor la de los ayuntamientos se habla de los presupuestos porque al final leyes sin financiación no

y la necesidad de reforzar los programas de apoyo a las víctimas de violencia de género por tanto esta iniciativa entendemos que ahonda en los retos a los que nos hemos comprometido y nos empuja a ser vigilantes y continuar trabajando por lograr el objetivo compartido en las instituciones en las que estamos todos los partidos políticos aquí presentes creo que compartimos el objetivo real de llegar a una realidad

históricamente como venía diciendo se ha venido trabajando de modo coordinado estas entidades tanto emakunde como eudel en el marco de los diferentes planes de igualdad desde la aprobación de la ley vasca para la igualdad en el dos mil cinco se viene firmando un convenio entre eudel y emakunde que realiza un trabajo colaborativo a nivel municipal de tal manera que se financian proyectos clave en relación con las políticas de igualdad

este convenio ha posibilitado la creación de la red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres berdinsarea cuyo fin es impulsar

a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres a través de esta red se pretende mejorar la respuesta local en la materia y que la misma sirva de nexo de unión entre estos y otras entidades supramunicipales esta misma legislatura se ha recibido en todos los ayuntamientos la guía para integrar la perspectiva de género en la nueva normativa municipal elaborada en el marco de la red de técnicas y técnicos municipales berdinsarea eudel y emakunde

una nueva herramienta didáctica y procedimental para incorporar las evaluaciones previas del impacto en función del género desde un primer momento en el diseño elaboración y producción

y algunos actos administrativos promovidos desde los gobiernos locales ha supuesto un importante avance para su aplicación en los procedimientos de la administración local puesto que ofrece recomendaciones articuladas para cada una de las fases del proceso justiziazkoa da aitortzea ere

en cuanto al contenido del acuerdo no me voy a extender más puesto que tanto la señora arana como la señora garrido

leído los puntos transados entendemos que recoge perfectamente tanto el espíritu de la iniciativa original como las cuestiones de respeto competencial y trabajo coordinado y consensuado entre diferentes instituciones que planteaba al inicio de mi intervención en euskera

está abierto me parece que hasta el seis de julio la convocatoria de ayudas sobre urbanismo inclusivo cuyo objetivo es incorporar la perspectiva de género en el planeamiento

distintos recursos y equipamientos del territorio o el incremento de la seguridad de las mujeres en los espacios públicos

que va directamente ligado también al segundo de los puntos que hemos transado lo ha inaugurado el consejero azpiazu y también la directora de emakunde planteando que los informes de impacto de género que han de hacer los diferentes departamentos deberán ser previos a la definición

el impacto transversal de las políticas públicas en materia de igualdad un gran paso a seguir en la línea de trabajo de países como suecia que encabeza el ranking del índice de igualdad

y de cara al futuro pues se nos plantean retos muy interesantes mencionábamos en el punto cuatro de la transacción la remisión a la cámara autonómica de la propuesta normativa comprometida

como la modificación de la actual ley de igualdad y la tramitación de esta modificación dará lugar nuevamente a un debate muy interesante donde esperamos recibir aportaciones

el movimiento feminista asociaciones de mujeres que esperemos que

de igualdad que afecten al conjunto de euskadi en aras de conseguir una igualdad real y efectiva

buenas tardes señora presidenta buenas tardes compañeras compañeros

pues profesionales de la iluminación y a ver quizás no nos explicamos bien cuando aprobamos la proposición no de ley

ilumine la sección destinada a arantxa tapia mejor que otras secciones pues para favorecerle y que eso afecte quizás a la independencia

no es otra cosa a la que nos referimos en aquella propuesta no de ley que aprobamos nos referíamos a cómo se elige

a la profesional que decide hoy mañana y pasado también lo que qué es noticia lo que dice todo lo que dice o hace la señora arantxa tapia que hace que sintamos además como cierta no sé preocupación por si le hubiera pasado algo pues cuando no la vemos en el informativo

pues es muy difícil que los informativos sean independientes porque las personas que los dirigen están elegidas a dedo

para nada pero sí su independencia porque sus puestos dependen directamente de quien los han designado porque quien te pone te quita

todo el mundo es profesional afortunadamente no es su profesionalidad lo que ponemos en duda lo que denunciamos es que los

como sucede en e i te be osakidetzan ere jakina denak dira

eta badakigu hala ere independentea izatea zaila dela porque es difícil romper con inercias de años con la autocensura pero el hecho de impulsar una carrera profesional basada en el mérito y la igualdad de oportunidades es ya un logro muy importante y también es muy difícil que un programa de informativos que son los que mayormente crean la opinión pública

a e i te be cómo va a ser independiente ese programa

por qué si las periodistas de e i te be no pueden dar su opinión en los informativos sí en cambio pueden darla en las productoras por qué e i te be ha privatizado o ha dejado en manos de productoras todos sus programas informativos no diarios

los y las profesionales de las productoras cómo pueden proteger su independencia hainbat galdera eta telebista egiteko modu bat agortuta

con esta iniciativa que hoy debatimos aquí venimos a certificar una vez más el incumplimiento sistemático por parte de la

o se esconden en discursos e iniciativas dilatatorias su nula intención de cambiar absolutamente nada en e i te be

o harían muchos gestos de indignación porque la dirección de la radio televisión pública ignore el mandato de un parlamento

como ahora voy a explicar de la misma manera que ignora a la comisión de control

y no es capaz de realizar una rendición de cuentas mínimamente aceptable todas lo sabemos y todas las que estamos aquí somos perfectamente conscientes de por qué ocurre así que nos vamos a evitar el cinismo disfrazado de buenas palabras

acordado está bien clara porque demuestra que la directora general no hizo lo que este parlamento le pidió en mayo de dos mil dieciocho es decir hace

a que en el plazo de dos meses es decir a finales de julio de dos mil dieciocho

que presentara una propuesta concreta para la promoción y desarrollo de la carrera profesional en e i te be

no la directora general pasado un año no ha presentado ninguna propuesta es un clásico de nuestra señora directora de e i te be

en la que se le solicitaba que en la elaboración de la propuesta esta que no ha realizado y lleva un año de retraso trabaje en colaboración con la representación sindical de las personas trabajadoras y con espíritu de consenso es decir por no empezar

y llevamos un año bien sencillo por tanto la directora de e i te be una vez más no cumple con un mandato parlamentario y aquí no pasa nada de nada no pasa absolutamente nada la verdad es que ya ni nos sorprende estamos ya muy acostumbradas de igual modo que no pasa nada

como ya le he dicho muchas veces y no es la primera vez que lo digo y elude contestar preguntas de nuestro grupo parlamentario somos ya

mayorcitas las que estamos aquí presentes pues para saber por dónde van las cosas

ni rendiciones de cuentas ni reforma integral y no se me indignen ahora que por decir lo que todas sabemos por favor poro estoy diciendo más que

que algunas no tenían ni tienen ninguna intención de hacer nada para que e i te be se reforme y eso es más que evidente la razón

con lo que hace y con lo que representa estaría bien que lo dijeran alto y claro para que también las profesionales del ente y la ciudadanía vasca se lo

más cercana a los estándares de televisiones públicas europeas dignas de tal nombre otras son más de modelos castizos y recurrentes en el panorama español y en nuestro compromiso por conseguir una e i te be más cercana plural igualitaria seguiremos trabajando dentro y fuera de la ponencia

hoy volvemos a aprobar por mayoría que la directora general de e i te be tenga a bien

de mayo de dos mil dieciocho y también que si tiene a bien venga en octubre a comparecer en la comisión a presentárnoslo y supongo que espero ya lo meto aquí por sí le llega que nos conteste a las preguntas que allí le formemos ahora veremos y cuándo lo presenta porque es muy dada a presentar informes a página por mes o sea que igual tenemos doce páginas y ahí se recoge todo y nada y entonces esperaremos a ver sí no tenemos que

señora directora de e i te be querrá que tengamos aquí una tercera vez a solicitarle de una vez por todas que cumpla con el mandato

le está exigiendo pidiendo por segunda vez besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arana andrea euskal sozialistak romero

ni la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta vez que tratamos esta cuestión bien sea en una comisión de control como ha citado la señora arana o bien sea en la sesiones de la ponencia donde ha sido objeto de tratamiento en más de una ocasión o en el debate de estas

lo que piensa el grupo socialista sobre la carrera profesional lo hemos dicho en multitud

resumir son los profesionales del ente quienes deben ser responsables de garantizar en cada información cada enfoque a cada noticia cada planteamiento sobre contenidos

que rigen la ley de e i te be referidos a la pluralidad y la neutralidad es la dirección de e i te be

y se va a desarrollar con plenas garantías y este parlamento es el que debe velar porque tanto los y las profesionales como la dirección desarrollen ambas funciones estos son los deberes de cada uno en cada ámbito pero por si queda alguna duda lo voy a decir como lo he dicho en otras ocasiones para el grupo socialista creemos que a día de hoy no se dan las circunstancias por las que los y las profesionales ni la dirección

y no lo hacen porque aun en nuestra opinión nos estamos refugiando en una normativa y en un hábito a la hora de trabajar que no responde a los criterios exigibles para desarrollar ese trabajo y ese desarrollo de la carrera profesional

de profesionalidad trasparencia e igualdad de oportunidades eso es lo que hemos pensado siempre

integral yo lo dije en la anterior ocasión en la que tuvimos ocasión de debatir una proposición no de ley podemos

a la dirección para que vaya dando pasos en colaboración con los y las representantes de trabajadores y trabajadoras en e i te be

el desarrollo de la carrera profesional son los deberes que nos incumben y que nos están ocupando

de reforma de e i te be de hecho ahí es el lugar donde los representantes

han dicho cuál es el modelo que tienen y nos han informado de cuáles son los problemas que ellos ven y cuáles son los obstáculos para el desarrollo de la carrera profesional lo dijo lab lo dijo ela lo dijo comisiones obreras y lo dijo también han dicho cuáles son los obstáculos y nadie ninguna de las personas aquí presentes desconoce cuáles son y saben también

con la manera de trabajar de esta dirección la mayoría pero que otros muchos es nuestra responsabilidad posibilitarlos a través de hacer valer y hacer efectiva porque ya llevamos mucho tiempo y se nos está esperando

radio televisión pública vasca que queremos entonces no vamos a eludir ninguna responsabilidad creemos que la dirección si quiere puede dar pasos en favor de esa carrera profesional puede ir trabajando con

pero también sabemos cuáles son los deberes que nos incumben a cada cual en otros ámbitos y ya estamos tardando en finalizar las conclusiones y en ponernos a trabajar

modelo de televisión pública objetiva plural neutral que forme informe y haga una sociedad crítica

de los medios de comunicación de la televisión pública vasca de la radio y la televisión pública vasca lo digo porque cada uno tendrá que aplicarse el cuento en cada ámbito nosotros nos lo vamos a aplicar en todos porque nosotros en la ponencia saben que siempre hemos contado

para garantizar la carrera profesional y así los pedimos y que cuando hemos tenido que dar pasos también en el consejo de administración para decir que no nos gustaba la manera de funcionar actualmente en la designación y en el desarrollo de los y las responsables de informativos y

nosotros hablaremos por las personas que están en nuestro nombre en ese consejo de administración hemos esperado a la reforma no hemos votado nada del organigrama a favor salvo el tema de tanto en la ponencia como en el consejo de administración hemos mantenido la misma coherencia no nos gusta esa manera de funcionar

funciona conforme a la igualdad de oportunidades pero creemos que la forma de cambiarlo tiene mucho que ver con el trabajo que

nuestro modelo de radio televisión pública vasca para el futuro y ahí ya nos vamos a tener que ir retratando espero que en un plazo muy breve hemos llegado

no sé si con la misma interpretación de que se nos vaya trayendo un informe de lo que se ha hecho hasta ahora lo que se ha hecho además lo ha anunciado un poco la señora

pero insisto eso no va a valer para el desarrollo de la carrera profesional de los y las profesionales de e i te be tiene que cambiar el modelo tiene que cambiar el modelo de la dirección tiene que cambiar el modelo del consejo de administración

la reforma y realizar los cambios normativos que proceden y luego

dependen del consejo de administración a tomar medidas porque si estuviéramos de verdad de acuerdo en eliminar determinadas cuestiones como el sistema de gestores que efectivamente pone

algo podríamos hacer antes de la reforma pero como de verdad entiendo que además de eso el desarrollo de la carrera profesional tiene mucho que ver con el servicio público que queremos prestar a la sociedad vasca a través de

audiovisuales creo que lo que tenemos que hacer como decía la señora arana es darnos prisa y no tener una vez que nos den los últimos estudios sobre

que hemos conformado todos ampliando las preguntas que se le iban a realizar dar un plazo corto para decir cuál es el modelo que de verdad creemos los grupos en este parlamento que permiten que la radio y televisión pública vasca cumpla con los criterios que debe servir a la sociedad vasca que están en esta ley y que han surgido con el traspaso del tiempo hay que servir

y hacerlo con una mayor neutralidad independencia y transparencia y hay que poner los medios y las reformas normativas para que eso sea posible y luego

dónde está el problema para que no se desarrolle la carrera profesional no tengo ninguna duda que cuando pongamos los modelos y las reformas normativas sobre todo de cuáles son las funciones de la dirección

todos los obstáculos para el desarrollo de la carrera profesional yo por lo menos visto el interés y sobre todo la comunión de ideas que hay y la unanimidad en este ámbito estoy convencida de que al menos en ese aspecto

que de aquí a septiembre podamos poner cuáles son nuestras propuestas de reforma
y cambios normativos muchas gracias eskerrik asko romero anderea euzko abertzaleak

emateko y efectivamente el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho hace un año poco más se adoptó se acordó en el pleno una propuesta en la que se pedía que en dos meses presentasen una propuesta concreta

con la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras con espíritu de consenso y que además que ese acuerdo se implementase en tres meses

en octubre el diecinueve de octubre del año pasado dos mil dieciocho eh bildu que

por parte del gobierno y entre ellas también de esta por parte de la dirección de e i te be

e i te be está abordando la preparación de una propuesta concreta para la promoción y desarrollo de la carrera profesional

aprobado considerando también los aspectos de elaborarla en colaboración con representación sindical de los trabajadores etcétera etcétera y decía que el plazo necesario si se quería seguir este proceso negociador y este proceso

de trabajo compartido pues debería de ser ampliado y desde entonces desde

tan sumamente importante y tan grave la falta de cumplimiento de aquellos dos meses iniciales pues viene hoy en junio en cualquier caso bitartean

ni yo ni nadie es dueño de toda la verdad mis perspectivas son siempre incompletas

gracias señora presidenta buenas tardes a todos la verdad es que uno no deja

en este parlamento porque cuando uno ve que hay una enmienda firmada y luego

y además parte de las intervenciones en las que se habla de performance pues para performance la que algunos han hecho

al pelo precisamente esa referencia cinematográfica porque la verdad es que muchas de las cuestiones que tratamos en este pleno

y yo efectivamente no había presentado enmienda porque hablaba la señora agirre de vestir

por ponerla en términos suaves hubiera puesto que cumplas ya pero eso por no ponerle la otra coletilla que se me ocurre porque claro

se estará trabajando pero ya se lo toman con calma ya se lo toman con calma y hablaba de del remake aquí del día de la marmota

y no e que no es por el apego es porque no se cumple es porque lo que se decide en esta cámara y lo que se solicita no se cumple

a los parlamentarios de bildu pero vamos el tono ha sido suave el tono ha sido suave porque cuando uno presenta una iniciativa que sale aprobada y un año más tarde tiene que volverlo a presentar

pues a lo mejor así se cumple y no la tenemos que volver a traer

si estuviera aquí la directora de e i te be nos hablaría

de que en la ley de creación del ente y el libro de estilo de e i te be aparece recogidos como principios

lo que quieran a que diría eso porque es lo que nos dice siempre es lo que nos dice siempre y es cierto en la ley de creación del ente

pero una cosa una cuestión es que aparezca en la ley de creación del ente y otra muy distinta con que aparezcan en la ley no es suficiente es que además se tiene que aplicar

se aplique y eso ya no está tan claro aunque se empeñen en decirlo en fundamentarlo y en que nos digan que nuestros teleberris están en la posición primera

no quiere decir que sean los más objetivos en absoluto en absoluto

criterios cuantitativos porque para hablar de qué importancia se le da a un tema determinado se dice que número de horas se dan sobre este determinado tema lo que no se dice es cómo ese tema determinado si es objetivo ese tratamiento o no es objetivo por lo tanto la objetividad en la información la imparcialidad no tienen

no tienen que ser soflamas que se lanzan una y otra vez desde la dirección sino que tienen que ser reales y como decían tienen que procurarse las condiciones para que sean reales y en eso que es lo que hoy debatimos aquí la objetividad la imparcialidad tiene mucho que ver con la carrera profesional y como dije en esta cámara también hace un año con relación a los profesionales también

se recoge esto se recoge la necesidad de una información independiente y lo que volvemos a debatir no por gusto repito sino porque no se ha cumplido es importante para garantizar esa independencia es necesario que los profesionales de e i te be vean reconocida su carrera profesional porque como se dijo aquí en su momento la carrera profesional no puede empezar y acabar en el mismo día es importante fomentar la carrera

eso es fomentar la independencia del medio no decir que son los más vistos

podemos considerar pertinente que algunos cargos como la dirección general del grupo la dirección de la televisión y la radio sean cargos de confianza hasta ahí podemos estar de acuerdo pero que cualquier cargo que determine o que lleve consigo un mínimo de responsabilidad en qué información se da en etb

sean elegidos a dedo eso ya nos parece excesivo y es que actualmente

todos ellos todos son cargos de confianza como decía la señora oregi en su momento se elegirán entre gente de e i te be sí entre profesionales de e i te be que los hay y mucho sí como se ha dicho aquí y cuando se elige a dedo pues se elimina la carrera profesional y la transparencia

otros criterios y además como se ha dicho aquí igual que se dijo en su momento que te pongan a dedo quiere decir que te pueden quitar a dedo también y ello

va a influir en la independencia a la hora de elaborar una información y la independencia es imprescindible en un medio público y no porque en el libro

los principios de pluralidad y objetividad en la información no porque lo ponga la ley de creación del ente no lo es porque la independencia es consustancial a un medio público un medio que debe estar al servicio de toda la ciudadanía y no de un gobierno determinado o de una determinada ideología y todas estas cuestiones es que lo han dicho

antecedido en el uso de la palabra es que ya las hemos debatido en esta cámara es que ya lo hemos propuesto en esta cámara y es verdad que las cosas pueden no hacerse de un día para otro pero hombre que tarden tanto y

lo que no puede ser es que creemos una ponencia para la reforma de e i te be que la propusimos nosotros pero que eso quiera decir que cualquier tema de e i te be no pueda debatirse que quede al margen porque entonces para las legislaturas futuras yo lo que le recomiendo a todos los grupos es oiga creen ustedes una ponencia y ya ese tema ya no se trae ningún tema más

de distintos temas y a partir de ese momento pues no sé de qué vamos a hablar en los plenos de pájaros y flores porque vamos creando ponencias de todos los temas y ya

yo creo que debe de ir paralelo a la ponencia y yo creo que el desarrollo profesional de e i te be

es algo que al margen de que lo tratemos y sea debatido también en la ponencia creo que se deben adoptar medidas por parte de la dirección de e i te be ya porque debe de basarse como decía en méritos y no

de la confianza de la dirección porque esa confianza en muchos casos puede ir ligada a sumisión y eso es contrario a la independencia porque es preciso que quien se encargue de fijar la línea informativa que quien decida qué es noticia y qué es noticia quién decida en definitiva

que abrían portadas en otros medios y en e i te be iba la octava ahora si hubiera sido

sin ninguna duda pero como era de mordor para arriba ay amigo entonces ya

hemos dicho en muchas ocasiones que eso

con esa independencia deben ser los criterios profesionales los que determinen la información

o como decía la defensa de un posicionamiento político concreto sea este más específico como la defensa del gobierno de turno sea

como es la defensa del nacionalismo como decía lo que se solicita aquí y por eso nosotros no habíamos presentado enmiendas porque íbamos a votar que sí se solicitó en mayo del año pasado como digo espero que esta vez que parece no sé por qué

los partidos que sustentan sobre todo la suya señora oregi que sustentan al gobierno van a aprobarlo pues a ver si esta vez sí

hasi zaigu porque no es de recibo que la dirección de etb no cumpla con un mandato de este parlamento y no es la primera vez que sucede además también ha ocurrido en otras ocasiones y tampoco es de recibo que miembros de la dirección de etb

consideren y digan públicamente que el mayor peligro para e i te be es precisamente este parlamento del que precisamente también emana la radio televisión pública vasca

dime de lo que presumes y te diré de lo que careces besterik ez

bueno voy a ser breve porque creo está todo más que dicho pero este debate

constata una vez más la ceguera y la sordera por parte del pnv y su directora general de e i te be que hoy trece de junio del dos mil diecinueve siga permitiendo que jefatura de informativos jefaturas de sección editores

no es de recibo se está o sea seguimos con el a dedo como en la prehistoria que era todo a dedo en la edad media

que vota que sí a que su directora general puesta por ustedes cumpla con un mandato aprobado en este pleno

se lo voy a mandar a ver si algún día revive ese programa tan maravilloso y

que va a quedar muy gracioso y no sé usted pero llegar a un acuerdo bajo mi punto de vista no implica no poder decir lo que una piensa siempre y cuando se atenga a las verdades yo entiendo que a usted no le guste el marrón que le ha tocado defender a la señora iturbe por activa y por pasiva yo lo entiendo pero

de ahí a que no quiera que nosotras podamos hablar y debatir y decir que estamos cansadas como decía la señora agirre de que no se esté cumpliendo ni por activa ni por pasiva

pues en términos de juventud

pues ustedes ya sabe que dilatan el tiempo como si de chicle se tratara

y todas las ocasiones en las que comparece elude contestar preguntas ni rendiciones de cuentas ni nada y habla usted de la verdad la directora general repetimos una vez más por si tenemos tapones en los oídos la directora general de e i te be no cumple con el mandato del parlamento

seguiremos trabajando dentro y fuera de la ponencia eskerrik asko arana

desde el escaño únicamente para reiterar que esto lo hemos aprobado hoy y esperamos que se cumpla sinceramente pero la dirección no es una podamos obligar a ese cumplimiento lo que sí podemos hacer los y las parlamentarias es ponernos a trabajar lo más rápido posible y votar las reformas que son necesarias para que la dirección no tenga posibilidades de seguir actuando con los criterios que actúa ahora nosotros

otras tienen otro modelo pero sabemos que esa sí que es la solución definitiva que es el cambio normativo y la reforma de e i te be ahora eso sí antes decía la señora

de e i te be le quería clarificar y en ese sentido hay partidos que pueden estar en el gobierno pero no apoyan esa gestión pero no hay manera de cumplir o hacer cumplir esos mandatos

que es la reforma integral y eso debemos de hacerlo cuanto antes por lo menos antes de que esta legislatura acabe espero que sí

y desde luego se dicen cosas que son valoraciones que son juicios de valor y también hay quienes aquí salen

y se acabó no estoy en absoluto de acuerdo en esta forma de trabajar y menos aún cuando tenemos abierto un espacio de debate y de trabajo en común donde estamos trabajando con lealtad con nuestras diferencias

de una manera bastante complicada diría y sin embargo hemos ido dando pasos y estamos caminando hacia esa reforma que todos queremos

y sin embargo salimos hoy aquí a sacar una tarjeta amarilla qué pasa

cuando empezamos con la ponencia después de que ya la ponencia estaba constituida

qué pasa ha llegado el momento de hacer las cosas como ustedes quieren pasando de los acuerdos pasando de los trabajos o los trabajos no están yendo por dónde quieren los resultados objetivos de los trabajos y de los acuerdos a los que se están llegando

entonces hay que buscar otra vía qué está pasando que no se pueden parar las cosas

temas y que hay que aprobar cuestiones en paralelo a la ponencia obvio evidentemente e i te be levanta

y hace su trabajo profesionalidad desde aquí mi reconocimiento a todos y todas las profesionales del medio

el otro día sin ir más lejos el lunes en la comisión de control

por unanimidad de cuestiones que no hay ningún problema en paralelo a esa ponencia se vayan trabajando pero es que hoy no estamos debatiendo una cuestión de fondo porque esa ya la debatimos el año pasado y la tenemos en la ponencia también dentro de los trabajos hoy lo que estamos la proposición de ley hoy tiene dos puntos uno que es que nos traigan un informe

que comparezca la directora para llamar a comparecer a la directora no hace falta hacer una proposición no de ley

y viene algunas aclaraciones por algunas cosas que se han dicho aquí y que me parece grave decirlas

se elige a dedo se coge a gente a dedo se ponen se quitan no hay puestos que podremos

porque es legítimo pensar en cambiarlo pero son puestos que son de libre designación eso no es a dedo eso es

que está en las instituciones en las diferentes administraciones y que es absolutamente respetable puesto que es legal y si no queremos que lo sea

es una fórmula legalmente establecida que se llama

designación y tiene unas características y tiene unos criterios y tiene una serie de cuestiones que hay que cumplir más cosas que se dicen aquí con toda la cara dura

es mentira ya está bien es mentira

y el consejo de administración también y es responsabilidad de este parlamento ahora

una iniciativa aquí queremos convertirlo en un juicio sumarísimo a la directora y a la dirección pues eso ya es otra cosa pero eso es su responsabilidad

no pretendo entrar en ese campo de juego quiero volver a defender el servicio público y reivindicar

creo que es importante que todos y todas seamos muy conscientes de lo que tenemos entre manos y sigamos trabajando en la ponencia bajemos el tono y vayamos a la ponencia donde sí somos capaces de trabajar

que sigamos trabajando allí y trabajemos dejándonos la piel haciendo propuestas llevándolas adelante y acordándolas es más fácil pegarse que acordar

lo he demostrado hoy firmando la transacción

intentando buscar un consenso que lo habíamos conseguido aunque en el debate parezca que esto es otra cosa mila esker

que mi capacidad de sorpresa se estaba agotando no

ilimitada porque es que señora oregi decir

es libertad dedocrática oiga mire que se elige

a dedo o sea que se llevan allí en el consejo de administración fulanito va a ocupar este cargo de gestor no no no hay una elección

no a dedo si le gusta más dedocrática

que venimos aquí hacer juicios de valor mire yo la verdad es que con lo de la comparecencia

pero no hubiera servido de nada de nada porque lo he dicho en muchas ocasiones la directora general de e i te be no viene a comparecer aquí

hace una conferencia siempre en dos tandas en la primera dice determinadas cuestiones le digamos lo que le digamos le preguntemos lo que le preguntemos cuestionemos lo que cuestionemos en la segunda hace la segunda parte de lo que no le ha dado tiempo en la primera siempre siempre

en dos tiempos con lo cual hubiera venido aquí pues a contarnos no sé cómo utilizaba los dedos para elegir a los profesionales

y le hubiéramos dicho lo que le hubiéramos dicho hubiera contestado lo que traía escrito es que es así es que eso no es un juicio de valor es que eso es repasar cada una

ningún respeto por esta cámara ni la directora y me voy a callar lo demás no tienen ningún respeto y que hoy tenga que venir esta iniciativa otra vez aquí es una muestra más de la falta de respeto porque no lo ha cumplido y porque no tiene ninguna intención de cumplirla ninguna y la ponencia

pero eso no es óbice para que no se puedan traer determinados planteamientos

se ha llegado aquí y yo claro que reconozco a los profesionales que hay en e i te be pero perdone que le diga señora oregi yo tengo probablemente

entiéndamelo bien más autoridad moral para el reconocimiento de los profesionales de e i te be que ustedes porque ustedes lo reconocen ahora pero cuando gobernaba el partido socialista cuando el director de e i te be era socialista entonces los profesionales desaparecieron se fueron todos a tele madrid a te uve tres desaparecieron todos porque entonces vamos las críticas a e i te be eran un día sí y al siguiente también un día sí por las audiencias y ya le gustaría a la dirección actual de e i te be tener aquellas audiencias ya le gustaría y bueno aquello era

para cerrarlo a cal y canto y sacar al pajarito de la jaula y venga que volase venga

que en el dos mil nueve los mismos los mismos y yo miren

claro que quiero que cambie e i te be claro que quiero que se apruebe esa reforma de e i te be

ese servicio público que pagamos todos los vascos en el que tenemos que oírnos reflejados todos los vascos cualquiera que sea nuestra ideología y que deje de ser la propaganda de un gobierno y de una ideología determinada y que se hagan programas en los que se mofen pagados y que cuestan mucho dinero de todos los vascos que se mofen de una parte de los vascos y por eso le digo mire yo

yo le sacaría esta tarjeta y si ustedes hubieran sacado esta tarjeta a tiempo probablemente e i te be ya estaría camino de ser lo que tiene que ser un verdadero servicio público muchas gracias